llanos anderea zurea da hitza señora presidenta desde el escaño simplemente

gracias a los grupos con los que hemos alcanzado la enmienda esta iniciativa nacía de una recomendación concreta por ello nosotros a la hora de elaborarla lo que pretendíamos es abordar ese aspecto concreto lo cual no quiere decir que

que aquí se han expuesto puedan ser objeto de un debate posterior o de planteamientos posteriores nosotros simplemente pretendíamos que en esa recomendación que se

que existen dificultades técnicas y económicas y que desde los poderes públicos lo que tenemos que hacer es intentar salvar todas estas dificultades y conseguir ese objetivo
de accesibilidad universal o al menos acercarnos a él nada más muchas gracias eskerrik asko